me decía eje importante los datos efectivamente muy importante por eso estamos aquí por eso mismo estamos aquí y por al ansia de poder manifestada ya por algunos y que rueda por la calle

cuando uno gobierna y quiere hacer cosas tiene que ir de frente y plantearlas de frente no por la puerta de atrás no hacer

por eso mismo estamos aquí porque nos parecen muy importantes los datos hablaba de la secretaría técnica sí

mucho respeto por las personas y mucho agradecimiento a las personas que han trabajado en años complicados

y les han contratado a ellas por lo tanto creemos que son unas personas que atesoran un elevado conocimiento y eso también tiene un valor y lo queremos reconocer a pesar de ustedes no esperaba menos de usted señora corcuera una portavoz socialista

ustedes que nacen con la patina del derecho de los trabajadores y

pero qué pasa tenía alguna duda había también alguna duda para pagarles que no se les ha agradecido ni el trabajo prestado

mandado a casa por la puerta de atrás señora

mezclan interesadamente órgano estadístico con órgano de gestión del conocimiento

porque les interesa no aclarar les interesa la confusión por lo que le he dicho antes porque están haciendo las cosas por la puerta de atrás

punto de nuestra moción que una cosa es

la generación u obtención de datos estadísticos y otra es la gestión

producir y gestionar conocimientos propios en materia de comercio a través de análisis

y estudios propios diseñando instrumentos de observación sectorial

el conocimiento en materia de comercio a través de actividades programadas y de ahí la necesidad de contar con el órgano de gestión que hablan ustedes en su plan del órgano de gestión y una cosa es el órgano estadístico y otra el órgano de gestión y efectivamente nosotros le preguntamos al señor consejero cuál era el futuro de ikusmer y

esperando estamos ni la una cosa ni la otra no digo que no

funciones siguen en vigor pero no sé si digamos vamos a

no ya está no ya lo ha dicho usted ya está suprimido ya está no existe lo ha dicho usted pues pónganse de acuerdo señorías

más alto pero más claro no y me remito a lo que nos dijeron y nos dejaron la documentación

ayuda no dispone de la fortaleza económica ni de las estructura organizativa de las grandes multinacionales

y decían pero les aseguramos que estamos en ello todo lo que esté en nuestra mano

nuestro futuro y nuestros empleos pero también necesitamos su protección

minorista una actividad competitiva y enriquecedora que proporcione un valor añadido a nuestras calles a nuestros municipios y a nuestras ciudades pero también decían que

de comercio les generaba muchísimas dudas primero

modelo de asociaciones que nada tiene que ver con la realidad de esta comunidad autónoma nada tiene que ver por eso le decía yo antes que este es un plan plantilla que vale para qué

no vale y lo siento mucho pero es que el modelo no vale y lo dicen

no han conocido mucho de lo que se recoge en el plan

y quiero para finalizar recordar porque esto va a seguir

promover la mejora y modernización de las estructuras y procesos de distribución comercial

no implantarlas promover fomentar la implantación de procesos de calidad y renovación de comercio

fomentar la implantación y señorías creo que

de que esto no va por aquí va por otro lado eskerrik asko lópez de ocariz anderea

desafortunada y yo creo que es tan evidente lo desafortunada de alguna de sus expresiones que no voy hacer hincapié en ellas porque creo que usted misma se dará cuenta que quizá se haya

en ese sentido decir que han cobrado y que por eso no merecen ningún reconocimiento hombre el trabajo siempre merece un reconocimiento el trabajo bien hecho más reconocimiento y el trabajo bien hecho en las condiciones indecentes a las que se ha sometido

requiere también ha dicho que claro ustedes no se han cargado nada simplemente terminaron contrato y no lo han renovado hombre una práctica que se ha venido realizando durante los últimos años

sin dar ningún tipo de explicación pues evidentemente sí es cargarse algo ustedes se han cargado

esta página web todos los servicios que se prestaban y todos los servicios conexos con la realización de esta página web y la prestación y la gestión de estos datos que realizaba la secretaria

a día de hoy quién va a realizar si va a ser el estadístico del departamento

quién gaitas va a ser el que haga estas funciones porque una y otra vez

la secretaria técnica con el observatorio y aquí no estamos hablando del observatorio y de ese equipo de expertos del mundo del comercio y de otros ámbitos que debían de encargarse de gestionar luego los datos

producidas por la secretaria técnica para convertirlas en instrumentos útiles para el mundo del comercio y eso no se arregla con un departamento de estadística o con un estadístico

a los comentarios que usted ha hecho sino porque creo que no solo se les debe un reconocimiento sino que se les debe una disculpa

absolutamente inaceptable que por parte del departamento no se haya tratado con sinceridad a estas personas no se les haya informado con rigor de su futuro

se les hayan dado mensajes contradictorios cuando no falsos y cuando no se han escondido de estas personas cuando preguntaban por su futuro yo creo que además de un reconocimiento se merecen una disculpa eta guk berriro esaten dugu

los despidos delante de la reflexión desmantelar lo existente por delante de presentar lo que se propone como mejora y en definitiva hacer una chapuza
que nadie a estas alturas entiende eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak

a unos términos que fuesen justos por lo que se ve se ha debido de malinterpretar porque interesa

nada hay una alternativa hay una opción de trabajo que es la que se está llevando a cabo por parte del departamento ikusmer estuvo siete meses sin funcionar la secretaría técnica

ni el sector se quejó ni del sector se recibió ni la más mínima

ni queja tampoco de este parlamento tampoco de los parlamentarios ni de nadie del ámbito de la política pasaron los presupuestos de dos mil dieciocho por una comparecencia nadie dijo nada nadie dijo nada señor casanova nadie nadie se quejó de cómo se suprimía el observatorio de los presupuestos de dos mil dieciocho por tanto no intentemos ser más papistas que el papa no intentemos reclamar para el sector algo que ni el propio sector

señora lópez de ocariz léase bien las intervenciones de hace dos días de todo el sector del comercio pero quién apoyó ikusmer quién

apoyaron ikusmer no no no lo que dijeron es que estaba bien que hubiese estudios que se realizasen estudios y por eso yo le aseguro que los estudios y los informes se siguen haciendo

estudios para la distribución comercial por lo tanto no se paraliza nada

lo que no va a funcionar es la secretaría técnica de ikusmer entendido así que no tergiversemos las cosas también quisiera decirle que vamos a ver yo les he leído los ejes fundamentales y el eje fundamental de la cuestión de los datos que ya el departamento

nosotros estábamos preocupados ya desde entonces pero ahora hay una propuesta

oiga vamos a reconocer un trabajo extraordinario maravilloso que luego el sector no lo dice

por el que esas personas y esas empresas licitaron ese trabajo está pagado tal y como se quedó en el contrato y las cosas hay que pagarlas de ahí

dar a dedo dar a dedo el contrato qué es lo que planea la de adición de bildu

dar a dedo eso es lo que ha pasado eso es lo que ha pasado

laborales esas condiciones indecentes que han tenido

vamos a ver y por qué nunca hicieron ustedes nada para que ese tipo de contratos no se llevaran a cabo por la administración pública

que primero convenia y luego lleva más de cinco años contratando a través de la administración y nunca ha habido ni una queja

nunca entonces no generemos problemas no generen problemas donde no ha habido problema no se convierta usted señora lópez de ocariz en un lobby por una llamada de teléfono y nos pongamos aquí todos

diciendo que qué barbaridades estamos haciendo con el observatorio de la distribución comercial no no lo admito y no lo comparto y ustedes hoy tendrán el apoyo de los votos pero no tienen la razón del debate ni del discurso

que están continuamente diciendo que la administración pública tiene que tener recursos humanos propios que no se saque y no se gestionen las cosas de manera indirecta hoy acaban de darle una lección a todos sus compañeros de a algún sindicato que se pone también muy estupendo de la muerte

y resulta que vienen ahora a decirnos que sí que sí que se gestione de manera indirecta y además han sido listos ahí y han quitado lo del dar a dedo que ya lo tenía puesto el pp yo creo que podemos ir sujetando el debate realmente en lo que importa y es que el sector comercial tenga los datos tenga información y tenga estudios suficientes para afrontar los retos de un hoy y de un mañana a medio y a largo plazo que se les presenta

del departamento de turismo comercio y consumo y por eso estaba preocupado el consejero desde el veinticinco de enero de dos mil diecisiete cuando explicó las líneas estratégicas del departamento y ustedes lo tienen negro sobre blanco otra cosa es que no quieran leer porque saber leer saben

entonces decirles que en la agenda del departamento está el comercio como primera preocupación y antes que nosotros ya ha estado el departamento con el sector del comercio

no tergiverse y no diga que no han participado del plan director todos y cada uno de los miembros que estuvieron el otro día euskomer euskaldendak y las tres gerencias

dijeron que habían participado del plan director óigaselo

y verá cómo todas y cada uno han estado en las reuniones de la consultora que hizo el plan director no tendrán las conclusiones en su mano
pero participaron de ese plan director participaron señora lópez de ocariz nada más eskerrik asko corcuera

no voy a repetir todo lo que ya hemos ido diciendo antes y cuál es el encaje que todo esto tiene que creo que es evidente voy a empezar

la disposición final primera de la creación de ikusmer

en la interpelación el señor consejero decía el funcionamiento del observatorio será atendido con medios materiales y recursos humanos disponibles en el departamento bien eso es lo que está recogido en el decreto de creación y luego por razones que creo que ya se han ido exponiendo aquí entre el otro día y hoy pues esas labores se sacan a concurso se sacan a concurso y se van atendiendo

puestos y lo que son trabajos y lo que son personas creo que son cosas diferentes y que no es bueno mezclar en ninguno de los casos y en este caso tampoco pues bien por esas razones que se han ido explicando esas

pero llega un momento en el que con la creación de este departamento específico que requiere a su vez la generación o la creación porque así vienen obligados por las diferentes legislaciones y normativas que antes he explicado del órgano estadístico específico el departamento decide asumir eso con medios propios como le mandaba el decreto desde el principio y además ponerse manos a la obra con el órgano

por tanto una vez más vuelvo a reiterar que yo creo que el camino es el que está marcado

enmienda y por eso la apoyaremos evidentemente eskerrik asko oregi andrea elkarrekin podemos garcía andreak ez du hitzik hartuko beraz

onartutako agindu hori no he bajado a esta tribuna

he bajado para pedir una vez más su integridad en la sanidad pública vasca

porque es cierto la registramos en el inicio de esta legislatura

referencia al convenio del año pasado pero miren es que cada cual marca sus ritmos y en base a diferentes variables decide cuándo y cómo debatir sus propias iniciativas y por eso hemos creído que hoy que este era el momento ideal y es que si en algún momento

de este centro en el servicio de oncología radioterápica en el servicio de radiofísica en los dos hospitales al menos sobre el papel integración

lo cierto es que poquito más hemos avanzado y bajo nuestro punto de vista una integración funcional debería culminar en una integración estructural

ez da es cierto en ese centro se están haciendo cosas que nada tienen que ver con la oncología que es precisamente el fin con el que se creó es una pena porque a doscientos metros tenemos el hospital donostia

aprovechando esos espacios de una manera más eficiente para relajar las listas de espera para aprovechar recursos y a otros doscientos metros tenemos biodonostia por eso hoy más que nunca creemos que debemos insistir

al cien por ciento gure ekimenean planteatzen genuen soluzioa

no queríamos romper el consenso no queríamos romper el acuerdo que había entre el grupo socialista y eh bildu sobre la publificación del onkologiko la legislatura pasada

durante cuatro años una postura tan clara con tanto convencimiento pues no tenemos por qué creer no tenemos por qué pensar que en unos meses

e insisto ha habido voluntad de acuerdo por parte de los dos grupos proponentes hemos trabajado una enmienda transaccional a la que era casi

hasta límites insospechados hemos sido más flexibles que el señor eguiguren repartiendo panfletos sobre la otan en el paseo de la concha se acuerdan

flexibles que la señora rojo con el fracking en cuanto a las explotaciones a las perforaciones en el territorio histórico de araba mucho más flexibles que ella porque tomaba una posición en el gobierno del señor lópez y la contraria en la primera legislatura del señor por lo tanto como digo flexibilidad hemos tenido mucha siempre con el ánimo de buscar un acuerdo y nos da mucha pena en serio pero al final ustedes el grupo socialista

que ayer se declaraban a favor de cualquier publificación hoy se han echado atrás eta malguagoak ezin gara izan

sin medias tintas sin medias tintas ustedes señores y señoras del grupo socialista han tenido en sus manos un regalo bien envuelto

pero no lo han querido por tanto ahora van a tener que posicionarse sin ambages posicionarse y explicarse horretarako

egun on guztioi compañeros y compañeras parlamentarias voy a intentar repetir lo menos posible la intervención de la parlamentaria eva blanco y los debates sobre este tema se han dado a lo largo de estos últimos años y la pregunta oral que hice

el quince de diciembre sobre la situación financiera del onkologiko de donostia que no contestó aunque hizo alguna referencias al peso de las personas realmente no es un tema que

tampoco es un tema en donde buscamos que más allá de los debates normales entre el psoe y el pnv en su pacto de gobierno se desarrollen los pensamientos libres e independientes de cada grupo de acuerdo con la coherencia de sus ideas y de sus posiciones solamente nos anima el

de nuevo la sostenibilidad financiera del centro del hospital onkologiko

la mejora de las prestaciones mediante procesos de integración y coordinación para los pacientes y las pacientes en tratamiento de cáncer guipuzcoanos y guipuzcoanas de la comunidad autónoma y de euskal herria que también van al onkologiko este es un tema para hablar con seriedad

y cuando hablo de peso hablo del peso de los hechos

los vascos y las vascas saben siempre que contarán con el onkologiko en plan integral y funcional de atención al cáncer de euskadi siempre ha contado con el onkologiko

es una referencia fundamental para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer en nuestra comunidad autónoma estas son las palabras y su peso real pequeño por no decir a penas ninguno que nosotros conozcamos en este momento el peso de los hechos ya los conoces dos mil trece dos mil catorce el parlamento vasco por mayoría propuso iniciar proceso de del onkologiko

presentar en el pleno de este parlamento o en la comisión de salud

no se ha escuchado de forma reiterativa a este parlamento señor consejero

a este parlamento y además se molesta a veces porque digamos cosas que no está de acuerdo con sus planes porque el peso real de los hechos son al fin y al cabo las prioridades reales de las políticas de salud que está desarrollando este gobierno eso sí tiene peso y no poco

porque el papel y la utilización de los medios de comunicación la llamada opinión publificada que no opinión pública

sobre todo en este campo de tanto peso para las personas de la atención al cáncer lo que tiene sobrepeso es no escuchar al parlamento

de oncología lo que cansa precisamente por lo pesado que es es que propongamos una y otra vez al menos en los últimos cinco años un asunto que no tiene el señor consejero

de hincarle el diente con valentía con criterios y con firmeza se prefiere lo fácil lo liviano bajo el punto de vista del peso real de la medida

que por cierto no se están desarrollando con el peso necesario que se necesita en estos momentos

del cáncer de mama para las mujeres que sí nos consta que existe hace más de ochenta años el onkologiko nació con vocación de ser parte de la red pública del servicio vasco de salud

a todos los efectos integrando y coordinando todos los procesos de detección diagnóstico tratamiento

e investigación sobre el cáncer en nuestra tierra y consolidar su papel de referencia en este campo sabemos que no es fácil

como todos los asuntos complejos se necesita inteligencia capacidad de gestión sensibilidad democrática presupuestos adecuados cada año

lógicamente un plan de publificación debe contemplar cronogramas itinerarios de ruta protocolos planes de distinto tipo como es la homologación y dimensión de la plantilla como es establecer la organización adecuada del papel que debe cumplir en la red de hospitales actualizar los equipamientos y tecnología

y me llaman los médicos del hospital onkologiko para decirme que la unidad de radiocirugía

no funciona se ha parado no hay presupuesto para su renovación

a los hospitales de cruces y basurto queremos decir con respeto y con firmeza que el peso de esta decisión es importante pero puede tener

si el señor consejero quiere que se respete su trabajo de gestión sus políticas de salud que sus opiniones tengan peso en nuestros debates políticos

nosotros somos la democracia en euskadi nosotros

pero el dinero público también está ahí el dinero de todos nosotros y de todas nosotras y si se deja de invertir los veintitrés millónes ya veintitrés y medio

estamos por la sostenibilidad financiera del onkologiko para todas

y para todos los guipuzcoanos y para todos los habitantes de euskal herria no estamos para promocionar indirectamente experimentos de privatización cuyos beneficios y su destino

estamos para prestigiar nuestros centros sanitarios para que tengan en la red pública una financiación adecuada

se sienta a gusto con su sistema de salud oye oye no te pases ya se siente que se sienta más a gusto porque podamos tomar decisiones

sindicales y políticos proponemos la publificación de lo onkologiko

a los que le aconsejan demorar la decisión le van a meter en un lío en un callejón sin salida mientras sacan beneficios desde las instalaciones del onkologiko

todos esta decisión es un buen asunto de peso en esta legislatura de bastante peso si el señor consejero no tiene complejos

y hace bien las cosas le vamos a apoyar y los compañeros y compañeras del psoe tienen que reflexionar

en un pacto político de gobierno nosotros no proponemos otra cosa que

exacto a lo que la parlamentaria blanca roncal propuso en los años anteriores no somos nuevos en estas cuestiones recogemos las cuestiones

que se han discutido aquí antes me dicen mis hijo el otro día quién manda en el parlamento en el parlamento manda la presidenta no no en esto de lo onkologiko y tal el onkologiko tiene cierto peso el pnv de donostia tiene peso los batzokis de donosti

aquí manda jon darpón a los socialistas

porque él tiene sus planes y no le parece bien que los demás tengamos otros planes y es que el parlamento está para que los planes se contrasten

para que las prioridades se contrasten para qué está el parlamento no queremos molestar a nadie

no puede ser que cada vez que busque su propia coherencia política

con lo que dicen los agentes sociales o con lo que décimos algunos humildes grupos políticos le vamos a apoyar y si el partido socialista en vez de embroncarse con el pnv simple y llanamente es coherente con sus propios criterios

y en este parlamento le vamos a apoyar pero no nos metáis en este lío son cosas muy sencillas de las que estamos hablando

de incoherencias absolutamente y dejemos que el señor consejero lidere asuntos en donde

horas dice hombre que va a poner en cinco meses un plan funcional

en este punto y nuestra posición va a ser obviamente la posición que hemos mantenido siempre y plasmamos también reflejamos

de referencia diagnóstico investigación prevención y tratamiento del cáncer en donostia y desde luego hay que reconocer su valor y es de justicia reconocer ese

de la kutxa que la asume la obra social en el año mil novecientos cincuenta y dos

fundación onkologikoa una fundación sin ánimo de lucro cuya actividad se limita a tareas de interés público cumple una función pública aunque

osasun arloan euskadin eta gipuzkoan bereziki desde hace más de veinte años

juega un papel importante dentro de la red sanitaria de euskadi el convenio

la posibilidad de prorrogarse durante cinco año

de salud por lo tanto en virtud de este convenio se hace cargo onkologikoa de la atención de pacientes

que proceden de seguros privados o particulares por lo tanto creemos que hay que destacar el valor del onkologikoa y su papel desempeñado como

oncológico único que es hacia lo que ha caminado claramente la integración funcional desde el grupo popular desde luego obviamente estamos

una titularidad distinta pero consideramos y así lo hemos defendido siempre que son instituciones absolutamente

la coordinación entre ambas entidades con el objeto de prestar una atención

a los pacientes de oncología la planificación también de la actividad

realizarse de una forma coordinada y conjunta que es lo que ha pretendido y ha sido el objeto de la integración funcional pero creo que también

la decisión de la integración funcional no obedeció a un mero capricho sino que fue fruto de un proceso de reflexión de un grupo de trabajo con profesionales de ambos centros y con el propio departamento de sanidad que

por parte de los expertos de los competentes en la materia sobre la atención oncológica identificar posibles ámbitos de mejora y se concluyó que la mejor opción era la integración funcional y esas conclusiones como todos ustedes conocen están plasmadas en diversos documentos nosotros hemos defendido y seguimos defendiendo que la integración funcional

atención más integral de carácter más homogéneo a los pacientes con cáncer a la vez que permite utilizar los recursos públicos de una forma más óptima eficiente

tratar de evitar duplicidades para ello se ha establecido un calendario de todo el proceso de integración funcional que comprende distintos aspectos que además han sido aquí explicados en múltiples también ocasiones por el propio consejero en la comisión de salud

radioterápica radiofísica hospitalaria gestión única de listas de espera

en función de la patología y el mayor valor que podría aportar cada centro integración de los sistemas de información registro único de pacientes

incorporación también de los profesionales en los comités tumorales únicos

potencialidades de cada uno de los centros con el objeto de avanzar hacia ese tratamiento

y más integral en ese sentido nuestra posición pues es la misma no hemos variado señor uria señora blanco también tengo que decir que

a lo largo de los cuatro años de la legislatura pasada mantuvo una posición pero tampoco fue la misma que mantuvo cuando tuvo responsabilidades de gobierno porque no se avanzó y el consejero anterior al señor darpón fue el señor bengoa del partido socialista y todos sabemos

en este parlamento en relación a esta cuestión el tema se agitó precisamente cuando hay un cambio en el gobierno y vuelve a ocupar el gobierno el partido nacionalista vasco en un pacto de coalición que aquí el lehendakari es el señor urkullu con el partido socialista

tendrá que dar cuenta de sus posiciones y en su caso de sus cambios de posiciones y qué las motiva si quiere hacerlo está obviamente en su derecho en relación a las iniciativas planteadas bueno hay una enmienda de transacción nosotros nos vamos a posicionar obviamente en contra y creo que no es ninguna sorpresa señora blanco señor uria la posición del partido popular vamos a defender la nuestra a nosotros nos hubiera gustado una transacción porque entendemos que el planteamiento

de totalidad presentada por el partido socialista y el partido nacionalista vasco es bastante similar había una diferencia nosotros

y una financiación suficiente y estable para garantizar esa prestación o un servicio de calidad integral pero sí que hablábamos de algo más que nos parece importante y que lo reflejábamos así en nuestra enmienda que es un análisis de todo el proceso de integración funcional

y también la evaluación de todos los aspectos ejecutados en ese cronograma que se estableció nos abstendremos en la enmienda del partido

en común y en aras a que pueda salir la enmienda

nuestra posición es una posición de coherencia y por lo tanto no creo que esta intervención suscite ningún tipo de cambio

sí gracias presidenta el tema que debatimos no es un tema nuevo se ha debatido en numerosas ocasiones en esta cámara pero además

de unos y otros la preocupación por tener un centro de referencia en el tratamiento investigación y servicio en oncología lo compartimos y lo defendemos los diferentes grupos políticos aquí o allí la calificación

la valoración de los profesionales es la misma o muy parecida

por todos los que estamos aquí y la percepción de los ciudadanos es positiva y optimista respecto al centro por tanto el deseo de que este centro continúe con su labor

las dos iniciativas que hoy debatimos de forma conjunta se refieren a dos asuntos por un lado la conversión

de oncología y por otro lado la petición de elkarrekin podemos de publificar el hospital onkologikoa de donosti

defendemos hoy y siempre un servicio sanitario público y de calidad y que garantice el derecho a la salud de todas las personas es lo que hemos defendido siempre y

nos hemos manifestado unas cuantas veces el dieciocho de diciembre del dos mil catorce blanca roncal portavoz socialista en esta materia dijo de forma textual los socialistas reconocemos no obstante la existencia de la concertación claro que sí

que prestan una función complementaria cuando la red pública no llega pero las empresas de gestión privada no deben ser sostenidas fundamentalmente y casi exclusivamente por el sistema público cuando esto ocurre así cuando su sostenimiento es con dinero público debe

para que la planificación de los servicios la gestión de los servicios la función y la misión ya que el sostenimiento lo es a través de los servicios públicos sea también de responsabilidad pública esta era nuestra postura aquel día y hoy repito esas palabras y las compartimos reconocemos que es un tema complejo que afecta

pero no con el servicio porque este no está cuestionado y que mientras todos compartimos la labor que allí se hace encontramos el desacuerdo en el planteamiento

es más que complejo que en ningún caso podría ser

hasta la situación de los trabajadores y su integración sin olvidar la garantía de la calidad del servicio en ningún momento el mantenimiento de la investigación

de la salud somos unos convencidos del servicio público y en este defendemos el carácter monográfico para tratamientos oncológicos y control de los recursos que se destinan además también estamos convencidos de que onkologikoa es una referencia en la

diagnóstico y tratamiento del cáncer y además de serlo los ciudadanos lo perciben así y un centro fundamental y de calidad que

a estas alturas del debate todos conocemos las posiciones de todos los grupos políticos podríamos volver a plantear y explicar la historia del hospital de basurto cómo era

proceso no carente de dificultades podríamos continuar repitiendo todos los debates ya mantenidos pero en nuestra opinión es importante dar respuesta a las iniciativas que tenemos sobre la mesa como ya

la sociedad ha evolucionado mucho desde que en el año mil novecientos cincuenta y dos inició su andadura

y apoyo de las administraciones públicas así como de las cajas de ahorros municipal y provincial hoy las necesidades sociales prioritarias son muy diferentes a las sanitarias puesto que las sanitarias las asumen los poderes públicos

que son importantes los pasos a dar y el consenso la colaboración y la complicidad se hacen necesarios para avanzar uno de los aspectos que aparecen

es la integración funcional tema ya debatido acordado e incluso puesto en marcha en su momento y con el que estamos de acuerdo de ahí que

todo lo dicho hasta ahora no choca con la enmienda de transacción firmada el pasado mes de diciembre a la pnl de eh bildu en aquel texto se proponía

de garantía de un servicio de calidad y referencia en el tratamiento de investigación del cáncer avanzar en la integración funcional

el plan oncológico estos tres puntos los compartimos en su día y los compartimos hoy y entiendo que la mayoría de quienes estamos hoy en la cámara también

en la que insistíamos en el desarrollo del plan oncológico nosotros hoy nos vamos a posicionar defendiendo nuestra enmienda a la totalidad porque recoge todos estos puntos que he indicado en este momento evidentemente presentábamos dos vamos a votar en primer lugar la primera enmienda presentada que es la primera enmienda presentada en el registro porque es así lo que

y por lo tanto se votará esa enmienda a la totalidad presentada ante la iniciativa de bildu por ser la primera registrada y de ser esa aprobada decaería la segunda enmienda a la totalidad que presentamos en conjunto con el grupo

no obstante yo creo que esta primera es más amplia recoge la cuestión mucho más claramente de todo lo referente a los protocolos a la importancia que tienen esos protocolos de integración funcional a seguir dando ese servicio de calidad y ser referente en el tratamiento de investigación del cáncer y por otro lado también la necesidad de desarrollar por parte del gobierno vasco ese plan oncológico

y estrategias asistenciales de todos los recursos de oncología de euskadi creo que hay que ir haciendo los pasos paso a paso de una forma importante sin empezar por el final sino
seguir en orden todo el procedimiento nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

zeintzuk diren bakoitzaren posizioak la señora garrido defiende la integración funcional pero no habla de la integración estructural que creemos que una cosa además conlleva a la otra

es nuestra intención bueno sí hablaba algo en su enmienda a la totalidad pero como siempre

cuatro años más en su enmienda decía que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a cumplir los compromisos adquiridos en relación con el onkologiko

adquiridos anteriormente o a los compromisos que se han adquirido en esta cámara porque han sido varios e incumplidos como ya he dicho en mi primera

bienvenida a los debates sobre temas de salud en su discurso

qué bien lo disimulan y qué quiebros ha tenido que hacer de un lado a otro para intentar salvar la situación que tienen ustedes aquí claro que están de acuerdo con muchas de las cosas que se han aprobado en esta cámara precisamente eso es lo que yo hoy quiero subrayar y están de acuerdo con nuestra

y están de acuerdo con la enmienda transaccional que hemos firmado lo que pasa es que no lo pueden decir pero están de acuerdo qué tragaderas tienen qué tragaderas mire voy a recordar unas palabras de la señora castelo que está muy cerquita de usted

decía literalmente la señora castelo y por tanto

para saber si otros tienen o no están legitimados para llamarme a mí incoherente

tienen la culpa y voy a enumerar iniciativas de la señora blanca roncal la legislatura pasada una interpelación una pregunta oral cinco preguntas por escrito dos solicitudes de comparecencia tres solicitudes de información una moción

con el posicionamiento siempre claro y a favor publificación del onkologiko

que fueron también bastantes iniciativas usted ha nombrado a la señora roncal se ha referido a algunas palabras de ella yo voy a nombrarle otras la señora roncal decía

a favor de la integración en la sanidad pública siempre que ha tenido que pronunciarse ha votado a favor ha votado sí

programa del partido socialista en el año dos mil dieciséis elecciones al parlamento vasco punto seis infraestructuras sanitarias

señora castelo cree que tengo argumentos suficientes para llamarles incoherentes

bastantes incoherentes incongruentes contradictorios y todos los sinónimos que se me ocurran hoy de verdad que hoy estamos legitimados para eso y para mucho

y si hoy el onkologiko no está en el sistema vasco de salud si hoy el onkologiko no está integrado en la sanidad pública vasca es gracias a los señores y las señoras del grupo socialista gracias al señor prieto gracias a la señora mendia gracias al señor pastor gracias al señor andueza que no está pero le deseo mucho ánimo para que explique lo que está pasando hoy aquí

gracias a la señora castelo a la señora rojo a la señora corcuera a la señora sánchez y a la señora gracias a todos y a todas ustedes y si algo queda claro hoy después de este debate son dos cuestiones uno que se ha roto el acuerdo que había la legislatura pasada que se ha roto el posicionamiento que había sobre la publificación del onkologiko eso ha quedado

que en el gobierno los dueños y señores las amas y los amos están en esta bancada porque ustedes son lacayos

señor darpón yo le agradezco

los esfuerzos que ha hecho en explicarnos los resultados en la atención al cáncer que

sistemáticamente a nuestra población siempre se agradecen he estado diez años evaluando el programa de cáncer

y conocemos el funcionamiento al menos de todos los hospitales de bizkaia pero siempre se agradece

por legitimar lo que ya sabemos que está legitimado lo que no conocemos es cuánto más el departamento de salud va a meter en el onkologiko cuando empiece a finalizar los periodos de amortización de la tecnología punta que tiene la unidad de radiocirugía que está obsoleta

con un déficit anual de unos cuatro millónes no da hay que hacer una inversión extraordinaria en el onkologiko

para la reposición tecnológica y mantener la punta de la capacidad diagnóstica que muy bien explicaba el señor

la punta de la capacidad diagnóstica terapéutica y detección precoz

no pequeña yo entiendo los problemas que los socialistas tienen en la organización de su pacto

yo solamente reivindico que no nos líen mucho la cabeza y que

la coherencia de los pensamientos son parte esencial de este parlamento porque si no nos volvemos un poco locos y locas todas no sabemos cómo pactar y con quién pactar porque hay poderes

no poderes ocultos no el departamento de salud que lidera

en este punto que no compartimos ni sus plazos ni sus prioridades ni cómo aborda la colaboración público privada o qué piensa

o el parlamentario orbegozo o la parlamentaria garrido que gestionar

es más sencillo que la gestión de una red pública integrada con qué ejemplos el sector público con tolosaldea

siempre es una competencia desleal con el sector público y siempre pierde el sector público

de lucro de beneficios siempre hombre hombre jota no hables así no te metas en películas de once varas siempre

siempre pierde el sector público porque siempre se descapitaliza más inversión

planes de integración bienvenidos sean todos laura garrido encantado compañera

planes de integración funcional si estamos de acuerdo si

la intención de crear una polémica innecesaria ni de carácter político

la polémica se crea por la incoherencia en los procesos de pacto comentaba con el parlamentario iturrate que siempre me da orientaciones en estos temas

el onkologikoa no está en el pacto como el derecho a decidir y

iturrate el punto cuatro uria el punto cuatro que no lo has leído no está el onkologikoa en el pacto

de facilitar la acción de gobierno uria facilitar la acción del gobierno

hasta dónde queremos tirar de la cuerda para organizar la necesidad

bien gestionar lo público y lo privado siempre es más complejo que gestionar lo público

conocemos los resultados del trabajo de cáncer no tenemos por ahora nada que decir

que estaba a huevo pues vamos a intentar a hacer un esfuerzo no solamente la bancada socialista que tiene su propia reflexión que yo supongo

militantes del pnv de donostia militantes del pp de donostia militantes

yo no sé a quién representamos a veces los que estamos y las que estamos aquí gracias eskerrik asko uria jauna

uria usted conocerá muy bien a sus votantes y los conoce y nosotros tratamos

al conjunto de la población guipuzcoana y al conjunto de la población vasca que

pero porque creemos que desde criterios de eficiencia sostenibilidad y calidad y en este caso asistencial es una fórmula que ha funcionado y que está funcionando

ha habido un proceso de reflexión y yo creo que dejemos las decisiones que afectan

integrado por profesionales expertos del onkologikoa del hospital donostia del departamento de salud

mejor decisión era esta integración funcional

nuevo señora blanco y señor uria además señora blanco usted que es muy rigurosa en repasar la hemeroteca usted sabe que esta

apareció en esta legislatura yo no sé si por casualidad o por convicción la pasada legislatura

socialista que no habló aquí para nada de la publificación del onkologikoa por lo tanto

justificado y creo que la integración funcional en los términos en los que se han planteado está bien está dando resultados y yo creo que

y que obedecen más a criterios meramente en algunos casos
oportunistas o meros cambios de posición pues creo que no es el camino besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

sí señora presidenta desde el escaño

nosotros creemos que en todo caso

está en funcionamiento su funcionamiento está garantizado está garantizado el servicio y un servicio de calidad

eso es evidente nosotros no hemos cambiado el discurso la señora roncal siempre ha defendido la publificación del hospital

pero tiene que seguir un orden adecuado no es el primer paso a dar puede ser último pero primero tienen que darse otros pasos

el realizar un protocolo correctamente el hacer ese plan oncológico donde se establezca un cronograma donde se haga de una forma ordenada

se llega ahí no puede ser el principio ustedes lo que quieren es poner el tejado con una pared

no señor hay que seguir los pasos y como último paso

en la integración funcional y en el plan oncológico para llegar a ese fin en eso no hemos cambiado la postura desde el principio nada más y muchas gracias

señoras y señores consejeros señorías como ustedes saben hace ya un tiempo hace ya unas semanas el grupo parlamentario popular presentó una proposición no de ley en el registro de esta cámara ante

profundamente despreciables y rechazables que consistían en lo siguiente de manera resumida y es que en el último año en pueblos y ciudades de euskadi se han celebrado más de setenta homenajes y recibimientos presos de eta una vez que salen de la cárcel cumpliendo su condena solo en el año dos mil dieciocho llevamos ya cuatro homenajes celebrados

de eta este hecho este acontecimiento

desapercibido son homenajes y recibimientos con la escenografía de siempre pasillos en las partes viejas de nuestros pueblos y ciudades pasillos con ikurriñas con la bandera de todos

en salones de plenos municipales en los que se cede el sillón de alcalde a quien ha salido de la cárcel recibimientos

con menores de edad con niños con quienes todos ustedes saben

que compartirán y que serán los protagonistas de la euskadi del futuro en definitiva la ocupación del espacio público para homenajear para ensalzar

a quien ha segado vidas y a quien ha proyectado también una imagen de euskadi profundamente negativa rechazable

reconocer y recordar la labor del colectivo de víctimas del terrorismo del país vasco de covite en el trabajo ingente y fundamental que está haciendo para visibilizar y para que no pase desapercibido

a lo largo de tantos años y tantas décadas de sufrimiento y de dolor de tantas víctimas

en definitiva de tantos girones causados a la sociedad vasca la sociedad vasca al conjunto no creo que nadie pueda negar que tuvo una posición mayoritaria

a veces los políticos a veces los parlamentos a veces

y en demasiadas ocasiones no estuvimos a la altura uniéndonos todos con la misma contundencia todos con misma firmeza contra el terrorismo pero lo que es una realidad

e indebatible es que la inmensa mayoría de la sociedad vasca siempre estuvo en contra del terrorismo siempre estuvo en contra de eta

en paralelo la banda terrorista hacía caso omiso

porque conviene recordar estas cosas eta no solo mataba en nombre de un proyecto político no solo mataba y asesinaba en nombre

los vascos eta cada vez que apretaba el gatillo cada vez que ponía una bomba cada vez que secuestraba a alguien cada vez que

se perseguía a alguien se hacía en nombre de euskadi

de los ciudadanos y ciudadanas de este país eta nunca hizo caso a la voluntad mayoritaria de euskadi por lo tanto eta hizo daño a las víctimas del terrorismo y hoy merecen

nuestro reconocimiento y nuestra memoria por cierto extensiva hoy permítanme también a jorge

junto a fernando buesa y hoy una vez que hemos sido capaces

una vez que hemos sido capaces de derrotar a la eta de las pistolas quienes hicieron caso omiso a la voluntad mayoritaria de los vascos

nos hicieron tanto daño una vez que van cumpliendo sus penas salen a la calle y pretenden el aplauso en la plaza pública pretenden el reconocimiento

pretenden ser aplaudidos y reconocidos y que además los demás que además el resto miremos para otro lado y aceptemos

ante esto que es profundamente inaceptable es probable que

que la hemos ido viendo a lo largo de los últimos años esta escenografía macabra escenografía de recibimiento y de homenaje es probable que responda a algo más que una macabra inmoralidad que lo es es profundamente inmoral recibir a alguien como héroe cuando

probablemente responda también a una necesidad de ese mundo ante una realidad que les ha superado y es que después de tantos años asesinando después de tantos años militando en una organización terrorista después probablemente también de tantos años en la cárcel salen a la calle y se encuentran con una euskadi que no esperaban

del día después de la vuelta de la cárcel quienes les han apoyado quienes les han jaleado pretenden compensar esa vida tirada por la borda con aplauso y con homenaje pero

que es relevante lo relevante aquí no es si lo hacen convencidos o por una estrategia determinada lo importante es qué hacemos los demás ante esto lo importante es qué hacemos quienes tenemos que ser representantes de una voluntad mayoritaria de los vascos contra eta entonces hoy también contra el homenaje y aplauso a quienes han hecho tanto daño ante estos acontecimientos

y loas al terror en definitiva por eso nosotros estamos convencidos que no podemos mirar para otro lado y por eso presentamos esta proposición no de ley y no podemos hacerlo primero por la memoria de las víctimas del terrorismo

el último que fue el último homenaje en andoain pocos días después del recuerdo

el domingo pasado se celebró un homenaje a quienes fueron los chivatos los colaboradores necesarios

antes de ser asesinado en las que alertaba y en las que reconocía que se sentía acosado y perseguido no lo podemos hacer por la memoria de las víctimas del terrorismo por supuesto pero no lo podemos hacer por la dignidad de esta tierra

no lo podemos hacer por la dignidad de tantos centenares tantos miles tantas decenas de miles de ciudadanos vascos que fueron capaces de superar el miedo y enfrentarse a eta

nosotros creemos profundamente en el estado democrático y de derecho

asistimos con serenidad al hecho de que el paso de los años vaya provocando el cumplimiento de las penas que provoque y que permita que quien hizo tanto daño después de haber pasado un tiempo en la cárcel salga a la calle

asistimos con serenidad ante este hecho lo que nadie nos puede pedir lo que nadie nos puede exigir es que asistamos callados ante el aplauso

y quien cumplió pena privativa de libertad quien pasó por la cárcel

tanto daño esto es casi una exigencia prepolítica o predemocrática esto es algo que nos define como sociedad desde nuestro punto de vista cómo reaccionemos ante esto igual que cómo reaccionamos ante

también nos define cómo reaccionamos ahora ante la ocupación del espacio público de la plaza pública por parte de quienes quieren aplaudir insisto

o porque señaló al que tenía que ser asesinado o porque apretó el gatillo después de que alguien le ayudara señalando al que tenía que ser asesinado como es en el caso

y este es el núcleo de lo que hoy queremos compartir con ustedes y de lo que estamos

lo relevante para ser capaces de construir una memoria que en cierta manera nos inmunice

el domingo pasado en andoain había como les decía antes niños y niñas el domingo pasado adolescentes chicos y chicas que no han vivido el terrorismo chicos y chicas

a quien ha cometido semejantes atrocidades chicos y chicas que van a protagonizar la euskadi del futuro que la van a protagonizar con nuestros hijos

chicos y chicas a las que esos aplausos y ese recibimiento inoculan también una idea equivocada de lo que es la convivencia en democracia

porque inoculan y traspasan el odio y no tienen derecho

a la generación futura no tienen derecho a hacer daño también a la siguiente generación del daño que nos hicieron a nosotros no hay derecho a que

son adolescentes crezcan creyendo que hay alguna justificación posible que

a nadie por defender una posición política no hay derecho a que le hagan eso a la generación que viene y estoy pensando especialmente en ustedes

responsabilidad tienen en esto quienes más responsabilidad tienen en no inocular ese odio a quienes vienen detrás a la generación futura los demás lo hemos tenido claro siempre y es que no hay grises matar está mal asesinar no tiene ninguna justificación y quien ha asesinado y ha cumplido su pena

sus seres queridos en el ámbito privado de su domicilio de su casa porque la pregunta que cabe hacerse también es

a quien rompió la disciplina de eta y decidió separarse de la organización por qué no se ha homenajeado nunca a ningún arrepentido

a alguien que después de su trayectoria criminal se puso en crisis y fue capaz de darle la vuelta a su trayectoria y rectificar y abandonar la disciplina de la banda algunos porque fueron asesinados como el caso de yoyes

otros no corrieron la misma suerte de yoyes pero fueron repudiados y otros

porque no quieren ese homenaje porque son conscientes del daño añadido que infligen pero hay que tener un mínimo de poso de dignidad

para actuar así cuando después de haber asesinado y haber pasado por la cárcel aceptas que te aplaudan en tu casa y que te aplaudan a pocos metros de donde hubo gente asesinada desde luego son muy irresponsables quienes te aplauden

pero quien sale de la cárcel así también es

y esto creo que también conviene tenerlo presente por eso

positivamente nos reconforta también la rectificación del partido nacionalista vasco y del partido socialista la rectificación que lleva a incluir en su enmienda el rechazo expreso a este tipo de homenajes rectificación que no existía

que coincide con la rectificación exigida también y defendida por podemos y por el partido popular en la proposición no de ley de origen y por eso nosotros pidiendo previamente el voto por punto de su enmienda de transacción

del punto primero del rechazo y nos abstendremos en el resto hoy era un día para haber sido escuetos claros y directos para habernos no habernos perdidos en vericuetos extraños en hoy era el día para haber rechazado esto

haber abundado en lo que compartimos y en lo que reconforta

y a la dignidad de la política también en euskadi nos quedamos con que este parlamento hoy va a rechazar

abrumadoramente mayoritaria que en las calles de euskadi que en nuestros pueblos y ciudades se reciba como héroes a quien solo merecen vergüenza

por parte de sus convecinos muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

denoi hace escasos meses

en este mismo parlamento explicaba que recibir

no solamente es ofensivo para la víctima y para la sociedad sino que es para la ética

pertsonak jasotzea ulergarria zela estas dos personas

memoria y convivencia esa ponencia en la que el mismo partido popular

esta cuestión no participa y señor sémper señor alonso con todo el respeto quizás el lugar y el momento para debatir de todo esto es otro desde elkarrekin podemos se lo hemos dicho

como en privado que participen en la ponencia que participen porque su voz es necesaria es necesaria para construir un relato compartido por toda la sociedad vasca un relato que por compartido

y esto se lo décimos mil y una veces a pesar de que estamos lejos estamos muy lejos

cuando traen una y otra vez estos temas al pleno incluso hoy pero incluso hoy con este debate que ustedes están trayendo le reiteramos la invitación con este debate que están forzando le reiteramos la invitación mire yo creo y lo digo con total humildad que hoy toca decir cosas incomodas

y no con la intención de herir a nadie sino porque son de justicia y porque creo que es necesario hacerlo para llamar a la cordura

que espera ansia y demanda la ciudadanía vasca esan dudan bezala gaur

que en elkarrekin podemos no hemos puesto todo de nuestra parte hasta lo que no podíamos

un acuerdo amplio lo más amplio posible amplio sí pero también evidentemente con un fundamento ético claro muy claro y que sea útil

gustatuko litzaiguke akordio zabala lortzea eta akordio zabalak egotea horrelako gaietan pero nos tememos que en este debate se pueda mostrar lo contrario se pueda mostrar a los partidos vascos a la gresca que haya reproches que se convierta la memoria y la convivencia en un campo de disputa partidista a pesar de que siempre digamos que hay que hacer lo contrario hoy toca debatir de cosas tan complejas como los límites de la libertad de expresión de la deslegitimación de la violencia

de los presos que han cumplido su condena del derecho a la dignidad de las víctimas pero se va a debatir mezclándolo todo confundiendo términos tomando la parte por el todo en nuestra opinión eso es algo inadecuado

y en relación con lo que subyace a todas estas cuestiones que he citado ahora mismo creo que hay una cuestión clave que es empatizar ser capaces de ponerse

de hacerse cargo de los sentimientos del de enfrente enpatiarekin lan egin behar dugu aurrean

no es algo difícil es fácil es fácil si se quiere si uno quiere ponerse en el lugar de una víctima es fácil hacerse la idea

egiten bazaio pero para eso hace falta querer hace falta querer ponerse en el lugar del otro y por desgracia en la euskadi del dos mil dieciocho en la sociedad vasca aún hay quien no quiera hacerlo citaba al comienzo de mi intervención unas palabras de elespe es fácil entender el dolor el sufrimiento

cuando se exalta la violencia o la pertenencia a una banda terrorista es un dolor un dolor añadido que no es justo ese sufrimiento esa nueva victimización no es ética y esto hay que decirlo

esto hay que ponerlo negro sobre blanco eso no podemos obviarlo ni podemos evitar

por eso en la enmienda que hemos acordado pnv pse y elkarrekin podemos se recoge ese rechazo

también lo que no se puede es generalizar que no se puede decir que siempre que un familiar o allegado acoge a un preso que ha cumplido su condena es un homenaje y sí

y de esa persona que ha estado privada de libertad que vuelve a casa habiendo cumplido su condena

reciban a su familiar erraza de ulertzea ere ama bat

quizás y digo quizás porque no ha sido acordarlo el matiz en que esa acogida debe realizarse no es

quizás esa acogida humanamente entendible debe realizarse en otro marco más discreto y con el entorno social entender esto que puede resultar polémico

tienen como fin la resocialización y la reinserción

que se rechazan los homenajes públicos homenajes que se hacen a un pasado violento y a la pertenencia a una banda terrorista y no en otros supuestos

de la deslegitimación de la violencia de memoria de reinserción del derecho de las víctimas a la verdad de justicia de reparación realmente es una buena enmienda y permítame que ponga encima de la mesa otra cuestión alguien puede explicar

a la convivencia en euskadi hacer homenajes públicos a personas que han causado un profundo daño

cómo puede ser que en el año dos mil dieciocho tengamos que seguir explicando que toda violencia estuvo mal que aún hoy tengamos que pedir ese mínimo de empatía que yo citaba al comienzo

tengamos que seguir dando vueltas con cuestiones básicas de dignidad humana necesitamos reconstruir la convivencia en euskadi necesitamos reconstruirla después de décadas de violencia y de dolor e injustificados y este tipo de homenajes públicos no solo no suman es que restan a la convivencia bizikidetza berreraiki behar dugu

pero también hay que poner la cabeza cabeza para no caer en el debate trampa como dijo en su día un exdirigente popular ya hemos señalado que ni todo acto de acogida que ha cumplido su pena es un homenaje ni solo hay homenajes dañinos a las víctimas de eta

no voy a abrir ahora esta cuestión pero creo que es evidente que en este país hay víctimas de muchos signos y todas ellas tienen el mismo derecho a la dignidad

tendremos ocasión en el futuro de plantear esta cuestión de un modo constructivo y por qué hace falta cabeza una cabeza fría porque sinceramente que el día

el ertzaina jorge díaz en el que hemos recordado a enrique casas también al principio de este pleno creo que no es precisamente edificante

a veces el mejor reconocimiento a las víctimas es trabajar para que haya un acuerdo y en este sentido quiero terminar y no por casualidad agradeciendo

y al partido socialista de euskadi la voluntad que han tenido para llegar a un acuerdo y creo que hacer un agradecimiento a otros partidos en un día como el de hoy

ni en andoain ni en donosti ni en bilbo ni en santurtzi se han producido actos

no ha habido reconocimiento son meras expresiones

personas que aprecian a estas personas personas que simplemente no les han podido ver durante largos años acogen a una persona en el seno del pueblo una persona que viene ya con la condena cumplida no se puede vincular con hechos de enaltecimiento glorificación o apología

rango hoy en día no es real es más diría que estos actos suponen una muestra de adhesión al nuevo tiempo político conllevan una reivindicación

única y exclusivamente democráticas para la resolución resolución que cómo no llama también a una nueva política penitenciaria actos de apego a un nuevo tiempo sin más vulneraciones de derechos humanos y en el que paulatinamente se vayan vaciando las cárceles

señores del pp tal vez preferirían que presos que han cumplido íntegramente su condena hasta el último día tengan un encaje imposible en su sociedad en su pueblo en su entorno que queden marginados frustrados

que no encuentren ningún arrope ni ningún arraigo nosotros no queremos que esto suceda no lo deseamos ex preso sea del signo o del motivo que sea sin un

es foco de otros problemas que estoy seguro nadie desea

los ongi etorris entiendo que al lehendakari le molesten

puede llevarnos a rechazar algo que no está sucediendo porque vuelvo a decir en ellos no se producen homenajes no se enaltece nada y no es que lo diga yo

de enaltecimiento a un joven de barakaldo su conducta no supone ningún riesgo

la audiencia nacional no aprecia delito de enaltecimiento y cito debido al inexistente contexto de violencia

la audiencia nacional aplicando el principio de realidad no hay riesgo el señor sémper nos dice que covite ha detectado setenta casos

y los jueces están archivando sistemáticamente estas denuncias presentadas por covite hasta el extremo de que su delegado de gobierno el señor de andrés se ha atrevido a pedir explicaciones al presidente de la audiencia nacional y al teniente fiscal de la audiencia nacional

independencia judicial y quién lo iba a decir que la audiencia nacional otrora martillo de herejes azote de terroristas asume ahora que estamos ante otra realidad diferente y son ustedes señores del pp quienes quieren ir más allá

porque su estrategia de cuanto peor mejor precisa impulsar procedimientos judiciales detenciones puestas a disposición judicial y tal vez nuevos encarcelamientos de quienes participan en estos actos quieren echar más leña al fuego quieren generar más sufrimiento

las cárceles y que además se alegra cuando esto sucede ustedes proponen que se vuelvan a llenar

lo que la audiencia nacional no hace y por eso precisamente consideramos que esta iniciativa es

porque no tiene que ver con la crítica política con unos hechos que no les gustan menos aun con salvaguardar el honor de las víctimas su iniciativa parte

que flojea su estrategia política de poner más obstáculos a un nuevo tiempo de normalidad política no hay caso lo dice la audiencia nacional pero es que

y lo ha dicho el señor erkoreka con meridiana claridad no habrá un informe de la ertzaintza porque no hay hechos de homenaje sobre se pueda redactar ese atestado y creo que el primer punto de la enmienda transaccional que hoy nos traen rechazo a homenajes que no son tales es profundamente contradictorio con esta realidad que está dibujando vuelvo a decir la audiencia nacional

rebate lo que dicen los jueces y rebate lo que dice la propia ertzaintza

ustedes ven homenajes donde los jueces no ven nada ustedes ven humillación a las víctimas hoy el pp quiere conseguir aquí lo que parece que no consigue en los tribunales y lamentablemente tengo que decir que el pnv y psoe y podemos se han prestado a este juego y por eso nosotros no vamos a apoyar pp ren helburua memoriaren eta bizikidetzaren

gracias presidenta bueno yo he de reconocer que me parece

nunca lo hubiera creído parece bastante curioso pero en cualquier caso

hacía porque quizás si ustedes consideran que este tipo de actos no son ni homenajes recibimientos tendrían que plantearse qué harían ustedes o qué haría esta sociedad si serían actos parecidos a estos cuando un violador vuelva a casa y se le recibiera con aplausos con recibimientos y pasillos de la familia probablemente generaría una mala

tampoco tendría que haber tenido mayor inconveniente en rechazar lo que pudieran ser porque no todos han sido

como usted plantea nosotros en cualquier caso por marcar la posición tenemos y no es ninguna novedad el firme compromiso de conseguir una convivencia cimentada en la verdad

amenazar acosar extorsionar o perseguir a cualquier persona y eso excluye expresamente consentir contemporizar permitir o excusar

y por lo tanto expresamente excluir cualquier acto que humille

que se aplauda a quienes perpetuaron durante medio siglo la extensión del miedo o la aniquilación del adversario y eso significa o debiera de significar una implicación activa y sin matices por parte de todos los poderes públicos de todos ante cualquier actuación que vuelva hacer daño a las víctimas

que se les produjo anteriormente significa también la necesidad de que cuando los condenados cumplan sus penas

de la cárcel siendo conscientes de ese daño causado justa e inútilmente

de estas personas y eso significa trabajar con todos los instrumentos legales a nuestro alcance para conseguir que ningún criminal que ha cumplido pena no solo

de que no es merecedor de ningún homenaje de ningún reconocimiento y ese sería un trabajo bien hecho que sepa que haber despojado de la condición humana otras personas para convertirlas en objetivos a eliminar

condenar su propia juventud y la vida de sus propios familiares que sepan con claridad que la euskadi que dejaron detrás de sus crímenes es justamente afortunadamente lo contrario

que es un lugar con el que se encuentran donde hombres y mujeres deciden en plena libertad a quien votan

en qué idioma hablan o cómo se quieren sentir todo lo contrario del proyecto de eta y los socialistas sabemos que esto que acabo de decir lo comparte plenamente el grupo proponente el partido popular sé que lo comparte en euskadi sé que lo comparte en navarra

pero obviando que lo que aquí nos trae a debate no lo respaldaron en la comunidad foral donde ni siquiera propusieron la implicación de todas las fuerzas de seguridad pero no quiero entrar en esos debates creo que en este momento son secundarios creo que esta es la oportunidad para recordar la tenacidad y dignidad de quienes hicieron a quienes les mataban la tenacidad y dignidad de quienes hoy hacen frente a quienes quieren pasar página

y quiero también aprovechar la oportunidad de volver a invitar al partido popular a que sume su voz a quienes en la ponencia de memoria nos hemos comprometido sin medias tintas

porque la verdad es que hubo ciudadanos vascos que decidieron organizarse para asesinar a otros ciudadanos vascos o de otros lugares de españa porque los consideraban enemigos

que respondieron a esa agresión desde la ilegalidad considerando a los primeros enemigos despojados de derechos y dignidad humana y hubo ciudadanos vascos y españoles la gran mayoría que vivieron alejados de esa realidad que la conocían solo por los telediarios por las portadas de los periódicos y unos pocos batallaron en silencio para denunciar cada vulneración en las calles

y varios miles más que resistieron el acoso la amenaza a la integridad física y la seguridad de sus familias y gracias a esa resistencia junto con la labor policial y judicial hicieron posible que euskadi sea hoy lo que es un lugar donde se puede defender cualquier idea y cualquier proyecto

y que tienen pendiente asumir que jamás debieron cometerlos y eso es uno de los

todas esas son verdades que se pueden constatar es lo que hila la propia existencia de eta solo hacerle un ruego al señor martínez usted ha usado unas palabras

yo le recomendaría le pediría que no las use josu elespe compareció en la ponencia de forma discreta y confidencial tanto es así que no quiso ni hacer declaraciones

respete su decisión bien ante estas verdades los socialistas reiteramos que ni una sola vulneración de derechos humanos ni una sola

pero ni una sola justificación ni explicación ninguna puede dar a entender que en euskadi

alguna vez estas cosas la democracia existe porque hay diferentes formas de entender un país y no es aceptable la aniquilación del que piensa diferente

que ha provocado eta o que se han producido con la existencia del terrorismo y junto a esta declaración de principios en donde consideramos a las víctimas en el centro de nuestras consideraciones y atendemos las diferentes opiniones que estas nos trasladan queremos trabajar para impedir que se vuelvan a repetir

porque todas las víctimas esperan que los asesinos reconozcan que jamás hubo una razón que explicara el daño que se les causó atendiendo a todas no a unas ni a otras a todas ese es nuestro último objetivo el objetivo de una nueva política penitenciaria nosotros también hablamos de la política penitenciaria

que es el camino que facilita la reinserción social que prevé la constitución porque

salvo algunas excepciones precisamente propiciadas por otra política penitenciaria dentro también de la legalidad vigente los presos de eta de forma mayoritaria renunciaron

penitenciaria y decía que salvo excepciones porque cuando coincidieron dos gobiernos socialistas

se propició la vía nanclares que abría la puerta a quienes quisieran desvincularse de la banda terrorista quienes lo hicieron fueron acusados de traidores pero lo cierto es que eta acabó desistiendo de la actividad terrorista ahora parece incluso que se anuncia

y sus presos ahora empiezan a asumir que tampoco van a conseguir la amnistía que algunos les prometieron ni el acortamiento de sus condenas los presos apuestan por acogerse a la legislación

a la individualización que rechazaron e incluso al acercamiento a las víctimas lo cual está muy bien entre otras cosas porque quienes antes les justificaban ya han asumido la legalidad y participan activamente en todas las instituciones cosa de la que yo me felicito sinceramente pero este paso

sobre las víctimas la solución a sus problemas las víctimas no están obligadas ni asumir el perdón o el reconocimiento tardío de ese daño la responsabilidad de su futuro está en ellos mismos en los propios reclusos que se tienen que enfrentar a una incómoda realidad no va haber salida para ellos fuera del estado de derecho ni en el que tampoco se ha abierto ninguna grieta para vencer al terrorismo

de cumplir la ley para buscar que quienes han delinquido y atentado se rencuentren con esa sociedad asumiendo su error por eso rechazamos que al salir de la cárcel

las víctimas se sienten doblemente victimizadas por eso creemos que la legalidad permite una política penitenciaria flexible

de eta y la evolución social y en este día tan especial para nosotros

alguna reflexión que mi antecesor como portavoz en esta cámara hizo aquí refiriéndose a

solamente entre nacionalistas excluyendo a otra parte de la sociedad fernando se preguntaba han mejorado las cosas con ello han conseguido ustedes que haya menos violencia en las calles

con el nacionalismo tengamos más tranquilidad más seguridad más libertad y hoy dieciocho años después en esta tribuna

grupo político y de tantos socialistas asesinados podemos decir que afortunadamente hemos conseguido superar el sectarismo recuperar el entendimiento entre diferentes

orgullo y sobre todo nos acordamos mucho más

asesinados y quienes hemos cogido el testigo tenemos el empeño de conseguir que nunca jamás

por haber eliminado a nadie por pensar diferente y que nuestro empeño y espero que el de todos también el de ustedes está en conseguir que todos aquí seamos capaces de decir

ninguna razón que lo justifique yo me alegro de haberles visto hoy como el año pasado en la ofrenda floral de fernando

con satisfacción pero creo que les queda todavía pasar el rubicón y llegar al otro lado creo que lo podemos hacer también coincido con usted a través de la ponencia
de memoria y nosotros también mantenemos el empeño en que eso se pueda hacer eskerrik asko

fernando buesa eta jorge diez memoriaren omenez baita josé ángel santos eta josu leonet

ensalzar o exhibir públicamente con esos fines a personas que han sido miembros de eta o que utilizaron o justificaron la violencia como medio para obtener fines políticos es absolutamente rechazable y avergüenza a cualquier sociedad decente lo digo con toda claridad pretender presentar como ejemplo a ciudadanos que señalaron a su vecino para que otros lo asesinaran es una bajeza moral pero además

y aumentan su sufrimiento y le someten por tanto a una nueva victimización que en absoluto merecen es por tanto

para todos los poderes públicos para todos los partidos políticos trabajar para que hechos de esta naturaleza no se produzcan y lo que es más importante impulsar

que hechos así no se vuelven a repetir pero con la misma claridad debemos recordar que no toda conducta reprochable es constitutiva de delito el derecho penal es la última ratio del derecho está reservado a perseguir y castigar los actos más reprobables de una sociedad democrática

taxativos y que no permitan una aplicación extensiva no es de recibo por tanto extender tipos penales de límites tan subjetivos como el enaltecimiento del terrorismo pretendiendo sobrepasar todo límite razonable no es de recibo forzar la interpretación y pretender convertir

toda conducta que nos produzca rechazo no es de recibo porque al final se puede acabar vaciando de contenido derechos fundamentales como el de expresión o de reunión

que lo digo con toda claridad son y deben ser objeto de especial protección por parte del estado y que desgraciadamente estos últimos días y lo digo con tristeza están siendo cuestionados

o por gestores culturales por todo ello nuestro planteamiento es tratar esta cuestión en términos de ética pública y moral democrática en lugar de recurrir a plantear ilegalidades

porque este tipo de actos que humillan a las víctimas podrán ser o no merecedores de reproche penal

lo que es indudable es que son reprobables desde la ética cívica y política es indudable que avergüenzan a las personas decentes lo digo con toda claridad es difícil construir convivencia democrática con alguien que considera que hechos así son normales

pero aun siéndolo vamos a seguir intentándolo vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir trabajando en ello porque nuestra obligación es construir convivencia no hacerla más difícil

no prohibiendo y restringiendo nuestra obligación es facilitar que quienes tienen pendiente una reflexión crítica del pasado y un reconocimiento del daño injusto causado den el paso y lo hagan

hablar más y gritar menos nuestra obligación es utilizar más la luces largas buscando el bien común

nuestra obligación es plantear exigencias democráticas es defender con firmeza los principios éticos es sentarnos en una mesa y hablar y dialogar

se llama hoy también ponencia de memoria y convivencia y sus puertas siguen abiertas para que todos los grupos de esta cámara participemos en ese trabajo

yo reconozco que puedo llegar a entender y entiendo que los familiares y amigos de alguien que ha estado preso ha cumplido su condena y vuelve a casa se alegren por ello puedo entender

y se esfuercen por facilitar su reincorporación a la vida normalizada esto último es además una obligación de los poderes públicos pero no puedo entender y menos compartir

pretendan exhibir públicamente su imagen y su pasado como un valor o un ejemplo ante la sociedad no puedo entender que se pretenda trasladar la idea de que lo que se hizo estuvo bien o fue justificado a esas personas les queremos decir con toda claridad que el camino que deben recorrer es justamente el contrario

y debemos facilitar que recorran y estamos comprometidos en facilitar que recorran pero mejor antes que después
y con toda claridad eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna

señor arzuaga recordaba el derecho que tienen de volver a su entorno social quienes han estado privados de libertad quienes han cumplido pena privativa de libertad por haber cometido delitos en este caso de terrorismo y que es natural

obviamente es lógico que el hijo que llevo

determinados años porque ha sido condenado por haber matado a otra persona quiera ver a su padre

cuando vuelve y es normal que su entorno más cercano quiera darle un abrazo

esto es lógico y es humano pero esto no es lo que está en cuestión señor arzuaga

sobre los sentimientos de cada uno evidentemente nadie es quien para meterse pero sí sobre el comportamiento en el espacio público que nos pertenece a todos cual este parlamento sobre su uso y sobre la exteriorización de determinadas manifestaciones podemos

porque yo antes le preguntaba por qué no se homenajea y no se recibe de esa manera a alguien que ha rechazado y alguien que ha renegado de eta y no voy a dar nombres porque en los últimos años afortunadamente tenemos varios casos por qué no se les recibe por su entorno es que sus familiares no se alegran

no tiene familia que esté contenta no tiene amigos es que

no tiene también entorno hemos visto algún tipo de manifestación de recibimiento a estos arrepentidos o traidores

determinado discurso claro asiente con lo de traidores es que es su dinámica en la que viven

lo que creo que es fundamental que interioricen

no podemos tolerar como sociedad democrática y que quiere afrontar un futuro mejor y construirlo de una manera notablemente superior y mejor a como ha sido nuestro pasado

con aplausos en el espacio público porque es verdad que supone para las víctimas del terrorismo una revictimización obviamente si a mí me matan a mi padre y al que lo ha matado

eso es revictimizar y un dolor insufrible e insoportable porque si no cuando se habla de reconocer el daño causado de qué estamos hablando de mera retórica cuando

del entorno de eta después de reflexiones supuestamente profundas dicen no estamos dispuestos a reconocer el daño causado

ostentación aplauso ikurriñas y aurresku

y quieren ustedes que nos creamos que es un reconocimiento sincero no

ni con lo que ustedes afirman políticamente no se corresponden los hechos

entre otras cosas tienen que dar porque la apelación a la presencia

convivencia quiero comenzar recordándoles que nosotros ya participamos en el primer momento de esa ponencia nosotros estuvimos

cuando teníamos claras tres o cuatro cosas fundamentales a través de las cuales poder hablar de otras o a partir de las cuales poder construir

porque lo importante no era reafirmarnos en nuestros posicionamientos éticos y políticos esos que defendimos también en la época en la que eta daba y daba bien y asesinaba

a estos señores y créanme que se lo digo y se lo décimos sin ningún afán

sino que se lo décimos desde lo más profundo de nuestra convicción llevan cinco años

nos podrían decir una conclusión una resolución que hable de memoria y de convivencia

de evacuar de esa ponencia una es que ni tan siquiera han sido capaces de acordar que recibir en el espacio público a quien asesinó

no tiene ninguna aceptación y la pregunta que quiero hacerles hoy que queremos compartir con el resto de formaciones políticas que participan tan activa y tan interesadamente en esta ponencia de memoria y convivencia sobre este tema ahora qué

ustedes nos dicen y hoy vamos a votar mayoritariamente que rechazamos este tipo de homenajes y recibimientos

menos eh bildu pero todos están presentes en la ponencia de memoria y convivencia

esto cómo va a votación amaitzen joan termino es decir ahora eh bildu
va a sumarse al rechazo porque mayoritariamente la ponencia están en contra del recibimiento

quien ha cometido semejantes atrocidades cómo funciona esto

cuál es la utilidad para la memoria y para la convivencia de esta ponencia si ni tan siquiera si ni tan siquiera han sido capaces de acordar en su seno lo que hoy vamos a acordar votando votando en público

si la indignidad si el recibimiento es público
el debate también tiene que ser público eskerrik asko sémper jauna elkarrkein podemos

explicar el fondo ético y humano de lo que se está debatiendo hoy

son cuestiones relativas a la ética y al respeto explico esto porque también hablando

consideramos que esto se resuelva ni con el código penal ni con la policía se resuelven

y con un diálogo más discreto que público con un diálogo que lo que busque sean acuerdos y no reproches un diálogo como he dicho más discreto que público que busque acuerdos y no reproches

tampoco van a convencer a nadie de que matar está hoy mal y estuvo mal siempre algo que es muy lógico del mismo modo que tampoco tiene sentido que se use el código penal para dificultar que las personas que han causado un grave daño a las víctimas en euskadi puedan reinsertarse cuál es el mejor sitio para ese diálogo

sí es la ponencia de memoria sí es ese espacio en el que estamos representados la mayoría de los grupos políticos de este parlamento y en el que planteamos un trabajo

de los grupos políticos en las intervenciones de hoy esto es un debate complejo

es ni negando la mayor de los homenajes pero tampoco saliendo con carteles en medio de ellos

atrás nosotros en euskadi hemos retrocedido veinte años la confrontación y la falta de empatía y la falta de respeto a las víctimas volvieron a tomar

ha sido triste es que poco aportó ni a las víctimas ni a la convivencia ni a la resocialización de las personas que han cumplido su pena lo que hemos vivido estos días

que hemos logrado abrir entre todos y entre todas pero sobre todo para tener más determinación de qué futuro

con memoria con convivencia democrática y con deslegitimación de toda la violencia

sí creemos que la manera de construir este futuro es a través en gran parte de la ponencia de memoria y convivencia también yo

no puedo entender algunas de las cosas que se me han dicho o que se me han insinuado

del intercambio de propuestas de textos de conversaciones de mensajes que ha habido a lo largo de esta semana probablemente algunos tendrían una posición más incómoda aún si cabe

homenaje de acogida homenaje y acogida de familiares

a mí me gustaría si puede usted venir aquí y decirme

hasta el final que el acuerdo sea lo más amplio posible

porque creo que hemos conseguido una muy buena y muy pertinente enmienda pero que no se diga tampoco que no ha habido intentos para que haya un acuerdo más amplio sinceramente yo creo que aquí el problema es de ustedes y que deberéis

antes mi intervención agradeciendo al partido nacionalista vasco y al partido socialista de euskadi

que nos permita salir de este debate con acuerdos y no solo con reproches cruzados entre partidos políticos y ojalá que en siguientes ocasiones pues logremos tener acuerdos más amplios

creemos y queremos a este país por encima de todas las cosas

con un presente y un futuro de paz de convivencia y de derechos humanos por lo tanto me reitero

en que creo que es buena la enmienda que hemos acordado entre elkarrekin podemos y también

facilita un acuerdo amplio en cualquier sentido eskerrik asko martínez jauna eh bildu

señor martínez por responderle rápidamente usted trajo una iniciativa en términos de rechazo a los homenajes que acotaba perfectamente al

le traía su texto para que una decantación que me parece lógica por parte del pse que se abrace a ella

y sabía cuál fue el resultado de la iniciativa de nafarroa es decir que nosotros

que ustedes vienen a facilitar que ustedes vienen a favorecer acuerdos amplios ustedes han decantado ese acuerdo y en ese acuerdo acaba entrando

quiero decirle entiendo de verdad que no le gusten estos actos pero le quiero decir también que no hay jactancia que no hay homenaje que no hay exaltación que no hay reconocimiento es su valoración pero quiero decirle que no se corresponde con la realidad y fíjese qué

que incluso efectivamente tengo que apelar tengo que algunas decisiones de la audiencia nacional para decir que no hay caso algunas decisiones y le voy a dar otra esta vez ante otra realidad que no ha salido en el debate y es en la realidad no de recibimiento sino de despedida a un preso muerto y la audiencia nacional dice no hubo proyección de imágenes de acciones terroristas ni tampoco hubo oradores que hiciesen discurso alguno en apoyo de la lucha armada destaca ni el aurresku ni el eusko gudariak

a la violencia la cuestión es se puede despedir

iturrate porque vuelvo a decir entiendo que no le gusten estás iniciativas pero lo que le quiero preguntar es concretamente porque no lo ha dicho si usted estiman que en andoain hubo

porque yo creo que claramente el señor erkoreka está diciendo que no lo hubo no hay elementos fácticos para que pueda haber un

que sostenga esa posición y le quiero escuchar y fíjese que me congratulo que usted traiga la propuesta del uso extensivo expansivo abusivo

que pide además su abolición y es cierto también que estamos viendo la audiencia nacional cómo se está exacerbando el uso tipo delictivo pero casualidad casualidad no para enfrentar los casos los hechos los actos que hoy estamos debatiendo ni los jueces ni la ertzaintza dicen que ha habido actos de reconocimiento exaltación u homenaje y querría

claridad al respecto señor sémper usted dice que ha sido estos actos les da gran dimensión le molesta que se hagan en la calle en la vía pública usted viene a decir en cierta manera que la calle es de todos

tal vez quieran hacer estos actos de ongi etorri

que haya mucha gente que sea multitudinarios que participe

haga una visión sobre si la política penitenciaria que ustedes están utilizando no tiene cierto efecto llamada o

una política de venganza una política cruel una política en la que se basa en la incomunicación de la persona detenida en su absoluta separación de las relaciones sociales en la diversificación de cualquier tipo de contacto

con tal vez esto no ejerza en mucha gente un interés hacia

empatía hacia él tal vez cambiar esa política penitenciaria no traería otro tipo de reacciones también en este ámbito piénselo porque precisamente considero que es esa política penitenciaria la que está teniendo consecuencia directa en cómo están sucediendo estas iniciativas ustedes no tienen problemas con los homenajes es cierto ustedes a los perpetradores de graves vulneraciones de derechos humanos de su responsabilidad no tienen ningún tipo de

no ha pisado la cárcel ni un minuto a esta gente se la indultado

y precisamente por eso les digo que esto también tiene un impacto en las víctimas cómo no en

insulta y humilla a las víctimas y por eso considero que ustedes ustedes no tienen ninguna legitimidad para dar lecciones de reconocimiento y reparación a las víctimas

a la audiencia nacional pero creo que se equivoca usted en el análisis ninguno de los que hemos firmado esta enmienda estamos hablando

lo estamos hablando desde el punto de vista de la dignidad de las víctimas y de la ética y del comportamiento sano y democrático no desde la tipificación penal que puede tener usted la razón y nosotros no hablamos en la enmienda de delitos ni del código penal estamos hablando de ética

de dignificar a las víctimas en las que entiendo que ustedes quieren también entrar en ese debate

por lo tanto creo que todavía por desgracia tienen ustedes alguna atadura que como le decía antes les impide cruzar el rubicón y yo entiendo los problemas internos que puedan tener y espero que cuando se decanten definitivamente ese debate que se anunciaba hoy respecto al fin definitivo de eta

lo deseo de verdad pero nosotros lo que hemos querido hacer aquí con ese tema de los homenajes porque como le decía antes si usted considera que no son homenajes los actos de bienvenida

en condenar los actos de homenaje que se puedan producir no tendría que tener ninguno

están haciendo o propiciando y olvídese del tema de la audiencia que nosotros no estamos hablando desde el punto de vista penal se lo ha dicho el señor iturrate se lo ha dicho el señor martínez estamos hablando de ética de algo que estamos hablando mucho en la ponencia

sémper no son cinco años lo que está en vigor la ponencia de memoria es en esta legislatura

fue hace dos fue hace dos cuando estos señores no estaban en esta cámara por cierto allí se hizo y en cualquier caso hay una forma muy simple para que usted conozca cómo funciona la ponencia de memoria tiene las puerta abiertas entre usted

y sabrá cómo funciona la ponencia de memoria es mejor que hacerlo de oídas de primera mano eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

señor sémper en estos temas el debate ha ido en un tono bastante razonable

su última intervención estos temas yo creo que sería bueno menos actuación y a veces incluso sobreactuación y más sinceridad a la hora de abordar los asuntos porque nadie ha reventado el suelo ético y usted a pesar de que lo ha repetido hoy aquí sabe que

quien ha traído el suelo ético a este debate he sido yo en mi primera intervención y lo hemos hecho siempre que hacemos referencia a la ponencia de memoria y

ustedes todavía tienen algo que aclarar en este parlamento y a esta sociedad y es porque estas señoras y estos señores están inhabilitados

a dialogar a hablar sobre convivencia sobre memoria en este país

son perfectamente hábiles y perfectamente legítimos para negociar acordar con ellos incluso violentando el reglamento para no perder una votación el número de efectivos que tiene que tener la ertzaintza la ertzaintza

de vital trascendencia para ustedes y para ellos y no tienen ningún reparo

incluso forzando el reglamento para que ante la falta de una parlamentaria no vayan a perder la votación un poquito más de sinceridad un poquito menos de sobreactuación un poquito menos de postureo cuando hablamos de preservar espacios de diálogo y protegerlos no estamos hablando de secretismo se lo decía al señor pastor las puertas están abiertas y además

no solo que les invitamos que es bueno y que es necesario que estén ustedes

lo décimos porque pensamos que es así porque creemos sinceramente que es así porque sus posturas tienen que ser puestas sobre la mesa y tienen que contar a la hora de adoptar acuerdos porque no hablamos de secretismo hablamos de preservar espacios para la construcción no hablamos de tener espacios para arrojarnos las palabras que para eso ya están los medios de comunicación

estamos para utilizar las palabras para construir porque lo que creemos que hay que hacer es trabajar más desde las instituciones y desde la construcción y menos desde la pancarta

ya le he contestado a la pregunta yo creo que su pregunta ha sido retórica porque toda mi primera intervención o una parte muy importante de mi primera intervención ha venido a responder a esa pregunta precisamente

yo no digo que lo que sucedió el otro día en andoain fuese un delito pero lo que sí digo es que produce

pública a mí me produce una gran vergüenza democrática yo lo que digo es que esos hechos son absolutamente rechazables desde la ética pública y yo lo que quisiera es que ustedes se uniesen a esa reflexión que se uniesen a esa reflexión y no quiero utilizar porque a veces según el tono que se

argumento parece que se está reprochando pero a mí

pastor en su primera intervención a ustedes a ustedes las parlamentarias de eh bildu les parecería razonable

a un maltratador o a un abusador sexual a un violador por mucho que haya cumplido su condena por mucho que tenga padres

porque ha estado en la cárcel cumpliendo su condena por violación y que sea recibido

que se pondere sin que se valore su hecho delictivo sino simplemente como un acto público de reconocimiento y de bienvenida a ustedes les parece no

no les parecería bien y pondrían el grito en el cielo y lo harían con razón y yo estaría a su lado haciendo lo mismo y manteniendo la misma postura por qué por qué eso no es aceptable en el caso de aquellos que han señalado a una persona a un vecino

a alguien que ha compartido con él calles probablemente

tiendas bares etcétera señalarle para que venga otro y le asesine es eso razonable desde el punto de vista de la ética y de la moral democrática yo creo que no
y espero que ustedes algún día también puedan decirlo con nosotros nada más eskerrik asko iturrate jauna

sí señora presidenta para solicitar el voto por puntos de la enmienda transada por los grupos

con que se pueda votar el primero y el resto de puntos por separado

solicitar el voto por puntos de la proposición no de ley origen del partido popular

nuestra proposición no de ley no simplemente si piden otros se puede votar por puntos porque eso ha pasado

pero si el sentido del voto del partido popular es igual en todos los puntos no podemos ir por puntos salvo que alguien quiera votar por puntos

la iniciativa ciudadana minority safepack anima a la comisión europea a cumplir con el mandato que le efectuó

a favor el llamado informe alfonso para proteger las lenguas y cultura de la minorías europeas

en la necesidad de una legislación europea vinculante que convierta

en hechos valores y derechos reconocidos en la carta europea de derechos fundamentales se trata ahora de insistir

europea el lema de la unión europea es in varietate concordia unidad en la diversidad el propósito de la iniciativa minority safepack es animar a la unión europea a cumplir

a minorías nacionales y lingüísticas y fortalecer la diversidad cultural y lingüística en la unión en el pasado la unión europea ha ignorado estas solicitudes

se contemplen a nivel estatal o por otras organizaciones internacionales